decía que en esta legislatura y en la pasada hemos ido dando pasos en el sentido de recuperar la memoria en la pasada legislatura se hizo un catálogo de vestigios del franquismo y en esta legislatura lo que pedimos los socialistas con esta iniciativa pedimos al gobierno que elabore un informe que en él no solo los hechos importantes históricos de la guerra civil y de los primeros años de la dictadura

también acontecimientos singulares de especial relevancia histórica y podríamos poner todos tenemos seguro en nuestra memoria ejemplos de ello

que está en un estado bastante decadente y con riesgo a perderse en algunas zonas y sería bueno que se hiciera una recuperación cinturón de hierro tenemos el recuerdo de las cárceles de larrinaga o de saturraran en ondarroa tenemos también lugares donde se fusilaron

el régimen republicano que son los muros de la vergüenza en algunos cementerios tenemos también batallas que recordamos como la batalla del cabo matxitxako o como la del frente de elgeta que últimamente se ha recuperado una teatralización

de dicha batalla y también están los bombardeos

creo que todos en esta cámara estamos de acuerdo es la necesaria transmisión de a las siguientes generaciones de lo que ocurrió

en el alzamiento este nacional el golpe de estado y en los años de la dictadura franquista nosotros con esta iniciativa instamos al gobierno a que por medio de este informe que se haga con criterios científicos por eso en la enmienda

transaccional que finalmente no han firmado otros grupos solo hemos firmado con el grupo nacionalista sugerimos al gobierno que utilice a la universidad del país vasco al instituto valentín de foronda para realizar este informe en base a criterios científicos

tiene el gobierno vasco para realizar un informe de estas características estamos seguros de que lo contratará fuera de sus propios medios porque no cuenta con medios necesarios para realizarlo y le sugerimos que

en la materia y además con experiencia de trabajo y colaboración con el gobierno en estas áreas también en el segundo párrafo instamos a que se haga la puesta en marcha de este informe y de esta implementación

eudel o bien ayuntamiento a ayuntamiento y sobre todo que se haga un patrón de funcionamiento es decir que estos itinerarios se fije qué tipo de protección tienen que tener todos los vestigios cómo se tienen que catalogar y cómo se tienen que identificar asimismo también recogemos

hasta donde yo conozco por ejemplo en el ayuntamiento de bilbao ha funcionado bien

se retiran todos los cuadros de los alcaldes los alcaldes franquistas y los alcaldes del régimen democrático y se trasladan a otras dependencias municipales con una interpretación contextualizada del modo de elección y las circunstancias históricas en las que representaron

realizar ningún coste específico ni construir ningún edificio

de lo que se trata con esta iniciativa es como decía al principio tratar de preservar nuestra memoria histórica la memoria de

y de los duros años de la dictadura que han dejado profundas cicatrices todavía hoy en mucha gente lamentablemente espacios de la memoria histórica que no conocemos muchos ciudadanos tampoco se hace demasiada publicidad de ello nos resulta a veces difícil el conocer cuáles son los hitos en qué fecha se han producido el visitarlo por lo tanto con esta iniciativa lo que tratamos es no solo de esa transmisión a otras generaciones sino también de

y recuperar esa memoria que creemos durante muchos años ha permanecido

al general de la ciudadanía y sobre todo y muy importante también hacerlo de acuerdo con los ayuntamientos de la misma manera que también de esa manera se hizo el dictamen por parte del gobierno con eudel sobre la retirada de los vestigios fascistas

un coste económico para ninguna arca pública porque todos somos conscientes de los tiempos que vivimos y tampoco es necesario hacer un dispendio

adecuada esto es en definitiva la enmienda

agradecemos al grupo que soporta al gobierno al grupo nacionalistas vascos el que hayan transado esta iniciativa con nosotros otros grupos mostrándose de acuerdo en el fondo del asunto no han querido firmarla porque tienen algunas discrepancias de matiz pero yo creo que lo resaltable en este debate y tampoco me voy a alargar mucho más es

lo compartimos todos y eso es lo que creo que hoy en el parlamento vasco

en valor nada más y muchas gracias eskerrik asko mendia andrea

prozesu judizialetara eta irakurriko dut literalki ofrecer acceso a las víctimas al aparato judicial y colaboración de la justicia con los procedimientos que vengan del exterior

egin zuen verdad justicia y reparación para las víctimas de la dictadura franquista significado y políticas públicas en la comunidad autónoma del país vasco hor ere

que las víctimas de la dictadura tienen derecho a la verdad la justicia y la reparación y han de reconocer las administraciones públicas proteger y garantizar estos derechos

sobre el derecho de las víctimas de violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos y de violaciones graves del derecho internacional

gracias señora presidenta señoras y señores parlamentarios buenas tardes

una provocadora con su falta de memoria histórica es usted una provocadora mire agradecerle la

mendia a favor a favor siempre desde el grupo popular de todos los estudios científicos especializados

histórico político cultural social de nuestra historia reciente o pasada a favor siempre del análisis riguroso esencial científico de nuestra historia pero eso eso precisamente científico y riguroso y por eso

en relación con las enmiendas que hemos presentado a esta proposición no de ley nuestra aportación desde luego era sustituir al gobierno vasco por

y rigurosas en relación con la historia y por eso nosotros poníamos en nuestra enmienda la universidad del país vasco

desde luego en eso nos centrábamos en que fuese un estudio desde luego sobre nuestra historia sobre esa parte de la historia que usted

la señora mendia ha explicado en esta cámara algo que nunca en ese sentido de científico y riguroso en relación con la historia el gobierno vasco en relación con este tipo de análisis históricos y

por lo que sabemos en relación con la historia la costumbre es

la historia es cuanto menos reinterpretarla o distorsionarla con muchos sesgos con muchos

y en ese sentido si hay que encargar un estudio de esas características que puede que sea

a los científicos a los historiadores y a los expertos nosotros aprobaremos la enmienda de transacción

promovida por usted y firmada por el grupo nacionalista vasco bueno aprobaremos la enmienda de transacción y desde luego si no certificamos

el estudio se hace por científicos por historiadores por especialistas pues nos parecerá que no se cumple el espíritu del acuerdo

insta al gobierno vasco a la elaboración de un informe independiente y completo en el plazo de seis meses y dice que puede que puede ser encargado a la universidad o al instituto valentín de foronda nosotros hubiesemos querido que se encargase

a esos expertos a esos historiadores que puede que ya veremos lo que hace el gobierno vasco para nosotros el gobierno vasco está descalificado

hacer un estudio historiográfico histórico en ese sentido pues entendemos que ya hemos visto cuáles son las calificaciones históricas especializadas profesionales

en relación con el instituto valentín de foronda está contrastada su actividad en temas como la dimensión social del proceso histórico en el país vasco contemporáneo las memorias de las víctimas en el país vasco contemporáneo

amplia andadura y además hay equipo y hay posibilidades y lo mismo

historia contemporánea del país vasco que está caracterizado por una gran vitalidad en todo lo que se refiere a la actividad investigadora pues los grupos consolidados de investigación

es imposible que el gobierno vasco haga un estudio de las características que usted le pide es imposible por el sesgo profesional desde luego

y por el sesgo político que impediría desde luego un equilibrio que se requiere en relación con estos procesos historiográficos

aprobaremos la enmienda de transacción y estaremos vigilantes y pendientes de que efectivamente sean científicos sean profesionales quienes hagan el estudio muchas gracias

buenas tardes evidentemente estamos a favor de que se recuerden los hechos históricos debidamente contextualizados debidamente contados y sin ningún tipo de tergiversación ideológica y sin ningún tipo de manipulación mostrar la historia es positivo

y a ser posible para no volver a caer en los mismos errores que nuestros antepasados en lo que se refiere al golpe de estado de franco la guerra civil y la represión franquista

positivo que se recuerde y que se haga un ejercicio de memoria histórica y que se recuerde a las personas que se recuerde a las víctimas que se recuerden los escenarios y

historia reciente por eso nosotros veíamos bien la iniciativa original del grupo socialista

a través de nuestra enmienda de sustitución de corrección que en lugar de que sea el gobierno vasco quien elabore ese informe tal como ha planteado también el señor barrio

cuyo departamento de historia contemporánea creo que todos reconocemos como uno de los más competentes del país y lo proponíamos porque nos parece que es la mejor forma de mantener la independencia y el rigor histórico que sean los investigadores que sean los expertos los profesionales los historiadores los que

encargar a la upv un informe independiente y completo y por lo tanto votaremos a favor de esa enmienda transaccional también se incluye la posibilidad de que este informe sea encargado

y por lo tanto nos vemos perfectamente representados recogidos en esa enmienda de transacción y votaremos a favor de ella eskerrik asko maneiro jauna

la historia siempre la escriben los vencedores y después de la guerra civil soportamos casi cuarenta años

mentiras injusticias y con un afán auténticamente fascista de reinventar a favor del bando ganador por eso aunque hayan transcurrido ya setenta y ocho años
del comienzo del alzamiento militar isiltasuna mesedez en contra de la legalidad jurídica de la segunda república continúan siendo necesarios

no solo el recuerdo y el homenaje a las víctimas del franquismo sino también estos itinerarios de la memoria histórica que sirvan para combatir contra la mentira de la historia de aquellos cuarenta años de dictadura hemos hecho una transacción con el grupo socialista pero como vemos se han sumado el resto de grupos que es lo que importaba nosotros pensamos que

de falsedades y de una historia única que evidentemente no era la verdadera en segundo lugar pensar en los que

la dictadura ni mucho menos la posguerra y que también puede tener cierta mala información por el ambiente de los cuarenta años de verdad única y de falsedad

pensando en el recuerdo y el homenaje a aquellas personas que murieron en defensa

y del primer gobierno vasco del lehendakari aguirre en el primer punto hay que insistir cuarenta años parece poco pero son dos generaciones y son dos generaciones que vivieron y que vivimos porque también a nosotros nos tocó un poquito

los sesenta y los setenta con una historia única con una historia engañada con una asignatura que se llamaba fen que era el formación del espíritu nacional que ensalzaba la gloria de los franquistas con la posibilidad de radio parís y de aquellos libros de ibérico como única verdad y esto

creo que es necesario porque la voz de cerebro de un pueblo después de dos generaciones de una única verdad

todavía tenemos que estar reclamando esa verdad histórica que nos quitaron durante cuarenta años

la verdad objetiva la historia objetiva para la gente que no conoció aquello y para la gente que solo tiene aquella historia

como referencias creo que es muy importante que esta gente en lugar de tener la sensación histórica que le transmitan sus padres o la historia de los cuarenta años tengan también unos

y sepan comparar entre la historia que nos engañaron en aquellos cuarenta años y la otra historia objetiva que es a la que intentamos llegar nosotros no tenemos ninguna duda señor barrio de la objetividad del gobierno vasco nosotros lo que pensábamos era

que hiciera el informe pero evidentemente no lo iba a hacer el gobierno vasco ellos serían quienes pensarían a quién se lo iban a encargar pero como siempre que se transa algo hay que dejarse pelos en la gatera

el valentín de foronda o podía ser la universidad pero nosotros éramos conscientes

algún tipo de instituto o centro de estudios que pudiera hacer una historia objetiva de estos cuarenta años sin necesidad de tener que recurrir a otros temas

el homenaje y el recuerdo que es la tercera pata de este mantenimiento de la memoria histórica el homenaje y el recuerdo

alrededor de la guerra civil entre los veinte y los cuarenta años y que

o durante la guerra civil creo que se merecen toda nuestra memoria y todo nuestro cariño

y por qué pelearon pelearon simplemente en defensa de la justicia de la libertad y de la ley y pelearon simplemente en defensa

tiene que estar siempre presente además de todo lo que hemos dicho anteriormente de la interpretación de la historia creo que es bonito que estemos todos votando lo mismo aunque también como decía la señora mintegi esto es un comienzo del camino y se puede llegar evidentemente

la iniciativa que traíamos los socialistas hoy a la cámara su objetivo principal por centrar porque podemos hablar de muchas cosas al hilo

era la preservación y el hacer unos itinerarios con un criterio científico es decir señalar los lugares que por su relevancia histórica por haber sido lugares de batallas de bombardeos de fusilamientos

guardar nuestra historia y también hacerlo de una manera que pudiera ser entendida no solo por los jóvenes sino también por cualquier visitante que tuviera interés en

y creo que es el momento de hablar de estas cuestiones y ponerlas encima de la mesa al mismo tiempo

es muy importante en estas tareas el consenso el consenso para avanzar

a unos nos gustaría ir más rápido otros no quieren avanzar pero lo importante de esta cámara es alcanzar consensos en la legislatura pasada se alcanzaron muchos consensos y muy importantes

pero creo que sirvieron para ir construyendo el futuro de este país

todos los grupos de esta cámara cada uno con su punto de vista avancemos

la iniciativa y el fondo del asunto puede tener otras preocupaciones pero este es el asunto que nos trae hoy aquí

yo no voy a hablar aquí como miembro del gobierno pero debo decirle que cuántos informes ha encargado este parlamento al gobierno vasco en todos los años de su andadura cientos

científicas muchas de ellas técnicas de mucha dificultad

ponemos acaso en duda los informes del gobierno y su grado científico yo desde luego no podré discrepar

pero desde luego poner en duda no y se señala el camino al gobierno

yo desde luego lo que estoy convencida es que el gobierno no tiene medios propios para realizar un informe de estas características

en la externalizaciones que hace el gobierno vasco trimestralmente que encarga fuera

y este seguramente también será encargado así lo esperamos yo por eso cuando puse en genérico encargar el informe desde luego lo que yo desconocía era que este parlamento según su enmienda transaccional y siento polemizar con usted en este asunto

su enmienda porque así como el señor maneiro en su enmienda habla de el parlamento vasco insta al gobierno vasco a encargar a la universidad del país vasco usted en su enmienda dice el parlamento vasco insta a la universidad del país vasco hombre no sé me parece un poco raro creo que nuestra labor es la legislativa y la de control al ejecutivo

vuelvo a reiterar aquí lo importante es que la mayoría de los grupos de la cámara estamos de acuerdo en preservar para las futuras generaciones estos itinerarios

explicable didáctico y que salga por consenso también con los ayuntamientos
con eso me quedo creo que es lo que tiene valor político de lo que hoy aprobamos en esta cámara esta tarde nada más muchas gracias eskerrik asko mendia anderea

legebiltzarburu andrea arratsalde on berriz ere precisamente consenso y como precisamente hay que buscar consensos no voy

que no estén para buscar consensos y se levanten de la silla

tendremos que buscar consensos para eso habrá que sentarse y hablar por lo tanto resulta un poco chocante que se nos diga que no los buscamos cuando se esta negando el diálogo

una lectura positiva y decirle vayamos a buscar consensos señor barrio entiendo que me llame provocadora lo entiendo perfectamente porque la verdad provoca la verdad cuando se sabe y cuando deja a la vista las tropelías

es algo que realmente tiene que resultar una provocación para aquellas personas que no lo quieren oír

al que fue alcalde de mi pueblo de lizarra fusilado fortunato aguirre

que no habían nacido cuando fue fusilado tienen sesenta y ocho años sus hijas gemelas sesenta y ocho años han esperado a que

fuera reconocido públicamente sesenta y ocho años han estado esperando y muchas de nuestras familias todavía están esperando a saber dónde están

de todo esto es de lo que hay que hablar y no desde la revancha ni desde la el rencor sino hay que hablarlo de una manera

para enseñar a las generaciones que es lo que ha ocurrido a pesar de que todavía no podemos llevar flores

a la tumba de nuestro abuelo porque no sabemos dónde está y a pesar de eso con ese discurso tenemos que ir a explicar que es lo que está ocurriendo lo que ha ocurrido

la memoria porque es parte de la verdad de la justicia de la reparación y de la garantía de no repetición la memoria no es ajeno a esos parámetros internacionales que están reconocidos en todo el mundo y que son la base de una paz duradera

sin justicia sin reparación y sin garantía de no repetición por eso digo que no es ajeno a lo que estaba planteando yo a esta iniciativa que es loable

es una iniciativa que nos parece muy positiva pero que nos parece que no solo llega tarde sino que es insuficiente todavía y si llega tarde

a seguir adelante lo que me preocupa es que a alguien le parezca que es una provocación hablar de eso eso es lo que me preocupa que alguien no quiera escuchar todo eso porque si llega tarde pero se hace adelante pero que resulte algo provocativo significa que todavía no se ha asumido

a día no se ha asumido no solo ya el reconocimiento de lo ocurrido en el pasado sino las actuaciones que están ocurriendo hoy en día día a día hoy cuando hemos tenido noticia de que una persona detenida ha sufrido malos tratos

hoy doce de junio de dos mil catorce que no estoy hablando

seguiremos provocando seguiremos provocando hasta que no se reconozca todas las verdades y todas las víctimas y es un tema que me llama la atención

no seré yo la persona que ponga en duda la cualificación de la upv

entidad académica en la que llevo trabajando treinta y dos años no seré yo la que ponga en duda ahora lo que me parece extraño es que se niegue de opiniones de expertos pueda haber opiniones de esas víctimas que sufrieron esa represión durante casi setenta años

se dé pábulo no se dé reconocimiento a las asociaciones de víctimas y realmente resulta por lo menos curioso extraño y llamativo

para que puedan contar su propio relato y su propia historia de los hechos a mi me gustaría ver aquí a las dos hijas gemelas

la señora mendia nos ha puesto sobre la mesa que es

hogares vinculados a hechos acontecimientos singulares con especial relevancia histórica ocurridos durante la guerra ocasionada por el golpe de estado militar la dictadura franquista itinerarios de la memoria histórica información histórica sobre los hechos acontecimientos

historiográfico un análisis histórico en relación con esas cuestiones nosotros hemos querido clarificar y lo hemos logrado porque al final en la enmienda

vincular a lo que había que vincular es decir que no es el gobierno como intermediario como facilitador en relación con lo que es el

la actuación a través de los órganos especializados hemos recordado las funciones y la calificación

en españa dentro de su área de conocimiento lo que ha sido resaltado por importantes publicaciones nacionales y extranjeras eso lo dice la upv de su propio departamento es decir una de las revistas

ahí vamos a entender vamos a analizar y vamos a ser los más rigurosos los más científicos en historia y nuestra universidad ahí está por eso pedíamos un pronunciamiento más decidido

vamos a votar a favor y efectivamente

todas las víctimas de la guerra civil se merecen un recuerdo todas absolutamente y efectivamente eso lo hemos dicho muchas veces eso lo reconocemos todos y eso es lo que tiene que pasar

no me fiaba del gobierno como historiador bueno pues normal

como médico efectivamente esa no es su función y por eso queríamos ponerlo más claro

que necesitan un poco más de rigor un poco más de sentido

la señora mintegi es una provocadora es decir

de un análisis histórico en relación con lo que estábamos hablando

manera más especializada posible y desde luego las tropelías ha dicho y las injusticias sobre

pero usted se olvida usted se olvida señora mintegi

y las injusticias sobre tantísimos años cometidas por eta es que usted se olvida y dice

pero usted tiene olvidos escandalosos usted no tiene la revancha ni rencor porque tiene olvidos escandalosos en relación con algunas de las cuestiones

usted y su grupo no han asumido el concepto la definición la necesidad histórica en este país de la memoria histórica usted no lo ha asumido y lo tiene que hacer

de dónde estamos de por qué estamos de nuestro compromiso con la democracia

con las víctimas en este país siempre usted no

le gusta eta la considera suya y particular usted no la condena no le interesa

tiene un déficit ético y clamoroso por favor

porque no puede ser que en ese sentido usted primero se vaya a abstener y segundo eche la culpa a algún grupo político de no sabemos qué cuestiones

recordarles que se fijen más bien en los puntos que tienen en común que no que en los puntos en los que divergen yo no voy a defender a la señora mintegi porque luego el señor barrio me dice que soy su abogado defensor y no lo soy

original es decir que yo creo que había que retrotraerse al comienzo de la pnl y habría que autofelicitarse de que estemos casi todo el parlamento

metáfora de la historia en sí una mentira repetida mil veces se puede convertir en verdad como todos sabemos y una mentira repetida durante cuarenta años se puede convertir en verdad y hoy mediante

de intentar enderezar aquellas mentiras de cuarenta años de intentar presentar una historia completamente objetiva y mucho

yo también pensaba señor barrio que no había que decirle como he comentado antes al gobierno vasco a quien tenía que encargar el trabajo de hecho en esta enmienda le recomendamos

uno de estos dos institutos o puede que elija un tercero o puede que haga un conglomerado de investigadores nuevo para

para decir al gobierno vasco que directamente adjudique a una empresa determinada o a un ente determinado

a alguien cuyo resultado fuera una historia completamente libre y objetiva cosa no muy difícil de hacer sobre todo comparado
con la historia que tragamos entre el año mil novecientos treinta y nueve y el año mil novecientos setenta y cinco besterik ez eskerrik asko eskerrik asko

las ayudas de emergencia social reguladas en la ley dieciocho barra dos mil ocho del veintitrés de diciembre para la garantía de ingresos y para la

en esta ley se señala que estas son prestaciones periódicas de naturaleza económica y subvencional destinadas a aquellas personas integradas en una unidad de convivencia cuyos recursos resultan insuficientes
para hacer frente isiltasuna mesedez hitz egiten ari da eta a gastos específicos de carácter ordinario necesario para prevenir evitar o paliar situaciones de marginación social

a la necesidad perentoria necesidades perentorias y urgentes de atención

motivada por causas ajenas sobrevenidas se trata por lo tanto de cubrir situaciones económicas de emergencia provocadas por un acontecimiento inesperado tienen un carácter finalista y se destinan al objeto para el que hayan sido concedidas su naturaleza es subvencional y por lo tanto quedan sujetas a la existencia de crédito consignado en los presupuestos en este sentido el artículo noventa y uno de la ley

que se consignarán unos presupuestos generales de la comunidad autónoma del país vasco los recursos económicos suficientes para la financiación de las cuantías de las prestaciones económicas previstas en la ley

y en concreto en el párrafo uno está recogido uno de los límites que en ningún caso podrá ser superado y que está constituido por las cuantías

en base a dicha previsión legal el decreto cuatro barra dos mil once de dieciocho de enero por el que se regulan las ayudas de emergencia social remite en su artículo nueve a una orden anual

con carácter anual para cada uno de los gastos específicos se fijan por tanto las partidas destinadas a cada organización local los gastos específicos y las cuantías anuales máximas destinadas a cada uno de los gastos específicos contemplados en las ayudas de emergencia social así la orden de veintisiete de marzo por remitirnos al año pasado del dos mil trece

en las ayudas de emergencia social y se señalan los criterios para la distribución de los créditos consignados para su cobertura y se fija el límite presupuestario esta orden eliminó como todos sabemos el límite patrimonial de los ocho mil euros pasando a cuarenta mil e incorporó también algunas cuestiones planteadas por eudel

de emergencia social y que los ayuntamientos en consecuencia tuvieran dificultades para sufragar las ayudas de emergencia social con las cantidades consignadas inicialmente por el gobierno vasco esos diecisiete millónes trescientos mil euros y por lo tanto esa cantidad

en ese sentido se dictó una nueva orden la de dieciocho de diciembre de dos mil trece por la que se financia la partida adicional de crédito para cubrir las necesidades del programa de ayudas de emergencia social por un importe de dos millónes de euros

consideramos desde el grupo popular importante que las órdenes tanto lo que se corresponde con sus trámites como su publicación se realice antes

para que los ayuntamientos puedan proceder a abonar las cantidades correspondientes lo antes posible

en este sentido está planteada la iniciativa del partido popular que dice expresamente que

insta al gobierno vasco a publicar en el mes de enero la orden del consejero de empleo y políticas sociales por la que se establecen las cuantías máximas a las que acabo de hacer referencia es decir se trata de adelantar tiempo y que los ayuntamientos puedan en consecuencia contar

últimamente están contando dado que como decía las órdenes correspondientes este año

se publicó en el mes de marzo si bien como decía se publicó una nueva orden incorporando un crédito adicional de euros este es el objeto de la iniciativa viendo las enmiendas presentadas y hemos intentado llegar a una transacción incorporando

tuvimos ocasión en el mes de octubre de debatir una iniciativa conjunta del grupo eh bildu del grupo socialista y del grupo popular en relación a que el gobierno vasco consigne la cantidad suficiente para garantizar todas las solicitudes de las ayudas de emergencia social que reciban los ayuntamientos ampliando en su caso si fuese necesario la dotación presupuestario

este fue el mandato parlamentario del diez de octubre de dos mil trece y como digo posteriormente se aprobó la orden en diciembre

en una postura absolutamente coherente siempre hemos mantenido que las ayudas de emergencia social y las ayudas sociales las prestaciones económicas previstas en la propia ley

lo necesitan y que en el sistema tienen que estar las personas que realmente tienen que estar en el sistema y por eso hemos señalado siempre y hemos defendido

que obviamente siendo la competencia del gobierno vasco la de sufragar y consignar las cuantías suficientes para dar cobertura a las ayudas de emergencia social así tenía que hacerlo y en ese sentido considerando que la cantidad también presupuestada inicialmente

este partido propuso a través de una enmienda concreta incrementar esa cantidad inicial en cuatro millónes de euros que tengo que decir que fue

hemos intentado como decía reproducir de alguna forma el acuerdo de diez de octubre de dos mil trece ha sido posible pero también tengo que señalar que el objeto de la iniciativa era lo referido a la publicación de la orden y de momento es la iniciativa que se someterá a votación y obviamente como creemos que es algo de sentido común y razonable

esperamos contar desde el grupo popular con el voto favorable del resto de los grupos

estatuan ahí están los datos datos certeros proporcionados por el propio gobierno vasco encuesta de desigualdades sociales dos mil doce

informes del ararteko uno de ellos sobre pobreza infantil que recientemente se ha presentado en este parlamento datu eta txosten

la propuesta del partido popular supone un pequeño avance pero pequeño no podemos negarlo porque poco conseguimos adelantando la publicación de la orden no consigue dar las coberturas suficientes a las solicitudes que existen y por ese motivo euskal herria bildu presentó una enmienda de adición una enmienda que lo que pretende es que esa orden que se publique satisfaga todas las solicitudes

y en este punto me voy a detener un segundo porque tengo que hacer una aclaración con respecto a la traducción de la enmienda de adición que registramos guk euskaraz esaten genuen

behingoz eskaera guztiak betetzeko diru partida ziurta dezala la traducción dice a que en el proyecto de presupuestos dos mil quince asegure como mínimo

y no como mínimo sabemos que somos insistentes con este tema pero tenemos que volver a recordar que la partida presupuestaria no es suficiente

de euros más en diciembre el dinero no ha llegado y los ayuntamientos han puesto de su bolsillo más de cinco millónes de euros y tenemos muy claro que aunque sabemos que no es un derecho subjetivo

es ampliable y si la consignación presupuestaria no es suficiente siempre se puede publicar una segunda orden el ejemplo lo tuvimos el mes de diciembre pasado se publicó una orden de dos millónes de euros más

año a año es un mecanismo sencillo y tremendamente eficaz se puede publicar esa segunda orden no en diciembre claro en julio

porque de lo contrario los ayuntamientos y también lo hemos dicho en varias ocasiones se ven obligados a redistribuir ese dinero con el que cuentan aminorando a su juicio unos aplican el límite patrimonial que consideran y otros le avisan conceptos a subvencionar no es justo

cuando sabemos que la responsabilidad es del gobierno vasco

muchísimo dinero si lo comparamos con una renta media familiar mucho dinero si lo comparamos con un sueldo mileurista muchísimo dinero si esos cinco millónes de euros los comparamos con las situaciones de necesidad que intentamos paliar con las ayudas de emergencias social

y razonable si comparamos esos cinco millónes de euros con los once que se han ido a la basura tras la construcción del puente del tav en zaratamo esos cinco millónes de euros son calderilla

los cinco millónes de euros pasan a ser la mínima expresión por lo tanto todo es relativo depende con qué se compare behin eta berriz

no entendemos por qué en octubre lo firmó y hoy no quiere volver a firmar el mismo acuerdo qué le impide hoy volver a instar al gobierno

pero le voy a explicar por qué el partido socialista no ha querido cambiar nada de su enmienda porque aquí cada uno tiene que hacer historia entiendo

que en las aes que van dirigidas a las personas

y también estamos de acuerdo en que firmamos esa enmienda en octubre del dos mil diez

para depender de la voluntad del gobierno no será mejor que nos sentemos a hablar y busquemos la formula de que el gobierno tenga que poner la partida sin que dependamos de su voluntad pues esa es la cuestión

sigan dejando afuera algunas cuantas personas y usted municipalista igual que yo y vemos lo que está pasando en los servicios sociales y usted vive en la comarca de ayala igual que yo

no atiende realmente a la realidad social que está pasando en este momento porque

o es que cuando cerraron kider no ha incrementado el número de parados en la cuadrilla pues sí pero el número que se computa es el del treinta y uno de diciembre

yo creo que la actual crisis económica con un incremento evidentemente en el desempleo hay una precariedad laboral de los salarios

y también hay gente que cobra salarios bajos y acude a solicitar aes

el incremento en el coste de la vida están siendo factores que contribuyen cada vez más a que las personas se acerquen a los ayuntamientos a ser demandantes de las aes

ojalá lo fuera pero no lo es por lo tanto son prestaciones

para hacer frente a gastos específicos de carácter ordinario o extraordinario

y leo textualmente necesidades primarias el alquiler intereses de amortización de créditos mobiliario y electrodoméstico reparaciones endeudamiento y otros gastos de mantenimiento eso es lo que cubren las aes la publicación de la orden de la

es verdad y establece cuantías máximas para cada uno de estos gastos y los criterios de distribución de las cantidades consignadas para los ayuntamientos gestores de las mismas

cada ayuntamiento opta por un tipo de gestión pero la mayoría recoge las solicitudes a partir del momento de la publicación de la orden

lo dice el consejero aburto en una respuesta que mi grupo formuló en el año dos mil trece por lo tanto es importante que la orden de las aes se publique cuanto antes sin embargo

lo preferimos por qué no han incorporado ese texto ustedes porque no han querido querían que nosotros

que en enero y en enero se hace la transferencia a los ayuntamientos he decir que el personal técnico de los ayuntamientos con los que yo he podido hablar personalmente

como en este así mismo en la comisión interinstitucional de inclusión social eudel los representantes que estaban allí ya han avisado

no iba a ser suficiente y avisan dicen avisan

solamente se van a tener en cuenta las personas perceptoras de la rgi y a los que están inscritos en lanbide al treinta y uno de diciembre del dos mil trece pero claro obvia cuestión es que en este momento son primordiales el número de perceptores totales a treinta y uno de diciembre en cada ayuntamiento de las aes ese es un dato muy importante y deja fuera a un volumen importante de personas

de prestamos y creo además que ha obviado la cosa superimportante

por lo tanto con la enmienda de adicción que propone eh bildu no es suficiente

creemos que la nuestra es mucho mejor es más completa y creo que en esto podíamos haber llegado a un acuerdo en una pregunta formulada por mi grupo ya decía el departamento que tenía intención de aprobar la orden de las aes

no ha sido así la orden de las aes del dos mil doce se publicó en diciembre del dos mil once la del dos mil trece se publicó en marzo del dos mil trece

espero que no pero bueno quiero decir por la continuidad evidentemente el artículo noventa y uno de la ley dieciocho barra dos mil ocho para la garantía de ingresos y para la inclusión social

anualmente en los presupuestos generales de la comunidad autónoma los recursos económicos suficientes para la financiación de las cuantías de las prestaciones económicas previstas en dicha ley

desde que se aprueban los presupuestos hasta que termina el ejercicio presupuestario la situación de necesidad pueden variar considerablemente y ejemplos tenemos cierres de empresas continuamente

de ampliar la dotación presupuestaria destinada a tal fin

forzamos que se dotara dos millónes de euros más pero no ha sido suficiente entiendo que vivimos una crisis profunda y demasiado larga

rápido de repente puede sufrir un empeoramiento progresivo

y te puedes ver abocado en la necesidad de pedir una ayuda y eso está pasando

entendemos y lo que queremos trasladar hoy en esta cámara es que en nuestra comunidad el aumento del paro es evidente en estos momentos y las nuevas situaciones de pobreza y exclusión social pues evidentemente también porque han provocado

perceptores de la renta de garantías y también un incremento en la demanda de las personas que se acercan a los ayuntamientos de las personas que demandan

no no no digo lo que no es porque yo voy a complementarlo cuantitativamente también en el año dos mil trece muchos ayuntamientos complementaron a duras penas las partidas de las aes

es que no se puede cuantificar con exactitud y no lo digo yo lo dice el acta de la comisión

algunos datos y por lo tanto tampoco se podría cuantificar con exactitud la partida económica

dos mil catorce pero eso no impide que podamos ver cuál es su evolución el gobierno haga un estudio vea cuál es su evolución y valore sí

un complemento adicional a esa partida los socialistas

planteando propuestas para afrontar las necesidades emergentes en la actual coyuntura de crisis económica partiendo de un análisis exhaustivo de la demanda real de las aes del porcentaje que se ha dado en los últimos años y basándonos en un diagnóstico social actual

y paliativas de situaciones sobrevenidas por la escasez de recursos económicos máxime en estos momentos que vivimos de crisis económica los datos permiten evidenciar los planteamientos que traemos a esta cámara la diferencia del gasto real con el presupuestado fue

de un millón seiscientos noventa y siete mil euros en el dos mil doce y de cinco millónes

en el dos mil trece para el dos mil catorce se han consignado veinte millónes y medio para las aes

considerando la ampliación presupuestaria de los dos millónes el departamento de empleo y políticas sociales asegura que está haciendo un estudio en profundidad para evaluar los aspectos de modificación del decreto regulador de las ayudas de emergencia social y dejando claro que el grupo socialista no pide nada que contravenga la ley de la que mana el decreto ni tampoco que se entre en colisión con la renta de garantías

nuestra enmienda de totalidad entendiendo que la propuesta original se queda corta y la enmienda de adicción una vez más quedaría al arbitrio de la voluntad del gobierno los socialistas planteamos

y que la transferencia de provisión de los recursos para cubrir por parte de los ayuntamientos cada uno de esos gastos específicos contemplados en las aes se haga efectivo en el mes de enero del año

y ayuntamientos así como el efecto de la demanda de las aes y

a fin de garantizar la cobertura suficiente para poder responder

que se produzcan a futuro con carácter coyuntural y como se consecuencia de situaciones de crisis económica como la actual evitando o paliando situaciones de exclusión social entendiendo que para las situaciones de carácter estructural tenemos

y esa es la enmienda a la totalidad del grupo socialista que vamos a apoyar eskerrik asko sarasua andrea

muchas gracias antes que nada quiero aclararle a laseñora garrido que normalmente

tengo que escuchar al resto de parlamentarios cuáles son sus argumentos para en función de esos argumentos decidir mi voto definitivo en principio votaríamos a favor

las ayudas de emergencia social son prestaciones no periódicas de naturaleza económica y subvencional

a gastos específicos de carácter ordinario o extraordinario

evitar o paliar situaciones de marginación social del total de los presupuestos para el ejercicio dos mil catorce le corresponden a las ayudas de emergencia social un total de veinte millónes quinientos mil euros cuantía

aunque las cuantías han aumentado el número de potenciales destinatarios de este tipo de ayudas también ha aumentado de modo exponencial debido a la crisis las cuantías de dos mil trece también resultaron insuficientes y por cierto todas aquellas iniciativas que se aprobaron en este parlamento tratando de instar al gobierno a que

o al menos el gobierno aunque incrementó finalmente la cuantía no lo suficiente y en absoluto lo que este parlamento le exigió estas ayudas van destinadas a gastos como la compra de mobiliarios o electrodomésticos de línea blanca gastos de alquiler reparaciones

de emergencia social entre otros la crudeza y la duración de la crisis han ampliado el número de personas necesitadas de este tipo de ayudas y se ha hecho imposible por parte de los ayuntamientos dar respuesta

con los requisitos para recibir este tipo de ayudas por ejemplo el año pasado quinientos veintisiete personas se quedaron sin este tipo de ayudas en el ayuntamiento de bilbao o en bilbao es por esto y teniendo en cuenta que según el artículo ochenta y ochod de la ley de

denegación y pago de estas ayudas y por ello es necesario que los ayuntamientos puedan conocer cuanto antes

de disposición teniendo en cuenta las consignaciones presupuestarias totales habilitadas al efecto para cada ejercicio presupuestario para que puedan ejecutar cuanto antes estas ayudas

todas las solicitudes necesarias que se adecuen a los criterios establecidos ciertamente ya debatimos esto en octubre de dos mil trece y al igual que entonces nosotros reiteramos que hay que habría o que debería haber dinero suficiente para cubrir

que tienen como objetivo no podemos olvidarlo luchar contra la pobreza y la exclusión social es cuestión de priorizar es cuestión por lo tanto de voluntad política

de decidir a qué se dedica el dinero

claro que evidentemente había o debería haber y deberá haber en el futuro es necesaria únicamente una voluntad política de priorizar

de luchar contra el fraude fiscal más y mejor de racionalizar el entramado institucional de reducir el sector público societario o de eliminar gasto identitario vemos a diario cómo se destinan importantes sumas de dinero a proyectos

sin ir más lejos como los diez millónes de euros que se pretenden aportar

de anoeta y que todos ustedes aceptaron por poner un solo ejemplo entre muchos que podríamos poner es por eso que podemos afirmar que esto no es solo una cuestión de dinero sino que sobre todo es una cuestión política es necesaria una gestión más eficiente de las ayudas que parte de una mayor disponibilidad de información por parte de los ayuntamientos sobre las cuantías anuales

una garantía de que todas las demandas podrán ser atendidas es necesario recordar que si bien las ayudas no son muy cuantiosas pueden suponer la diferencia

o no dentro del círculo de la pobreza ya se ha citado por otros grupos la transaccional que se aprobó en septiembre de dos mil trece

ya sabemos para qué sirvió el gobierno

ya sabemos qué es lo que decía esa transaccional en concreto se pedía al gobierno ampliar la dotación presupuestaria destinada a financiar las ayudas de emergencia social consignando la cantidad suficiente

de todas las solicitudes que se reciban en los ayuntamientos durante el año dos mil trece y se instó también al gobierno vasco a que en el proyecto de presupuestos de dos mil catorce

todas las solicitudes de las ayudas de emergencia social que cumplan con los requisitos establecidos para tal fin a esto se le instó

y lo cierto es que no se ha cumplido nada de lo que allí se firmó y se apoyó en relación a nuestro voto nos parece correcta la iniciativa original se centra en un asunto concreto pero sí que es cierto que nos parece claramente insuficiente en ese sentido pues la enmienda de totalidad del grupo socialista

es mejor más correcta es más ambiciosa y es más exigente aunque también por otro lado pues es cierto que ustedes no han llegado a ninguna transaccional y también es cierto que upyd no ha presentado ninguna enmienda de totalidad para poder firmar una transaccional mejor con alguno de los grupos por lo tanto y en función de los argumentos que se planteen pues decidiré nuestro voto

gizarte larrialdietarako laguntzak ditugu la característica fundamental de las ayudas de emergencia social es la necesidad urgente de atender una situación de carencia o estrechez de recursos económicos que se produce

por causas ajenas o sobrevenidas se trata de cubrir situaciones económicas de emergencia provocadas por un acontecimiento inesperado y por la escasez de recursos económicos provenientes de prestaciones económicas de carácter periódico

se utilizan como un recurso paliativo que evita situaciones que pueden suponer privaciones y o carencias de primera necesidad reiteramos hoy tal y como hemos hecho en todos los debates mantenidos en esta cámara relacionados con las aes que las ayudas de emergencia social no

la ley dieciocho barra dos mil ocho para la garantía de ingresos y la inclusión social enumera los criterios que habrán de ser tenidos en cuenta para la fijación de las cuantías otorgadas

uno de los límites que en ningún caso podrá ser superado son las cuantías máximas que tanto

se establezcan reglamentariamente en base a dicho precepto

remite a una orden anual de concreción de las mencionadas cuantías anuales máximas a conceder insisto tanto con carácter general como para cada uno de los gastos específicos

esan dizudanez pero una virtud sí que le voy a otorgar intenta superar la situación actual y conseguir un consenso más amplio en torno a las ayudas de emergencia social aunque con poco acierto según lo expresado por los representantes de los distintos grupos que me han precedido en el uso de la palabra

que no se corresponde lo que expresa por escrito lo que queda recogido en la

tampoco apoyaremos su enmienda transaccional aunque sí que cogemos el guante lanzado tanto por usted hoy en busca de ese apoyo y ese consenso como ayer

expresaban en las comparecencias que tuvimos ayer por la tarde los representantes de

para el desarrollo de la cartera de servicios sociales se requería de un amplío o máximo consenso para su definitivo desarrollo y que saben que tanto este grupo como este gobierno

señora sarasua le he visto un poco desfondada y haciendo un viraje considerable porque también además señalar el argumento de que no se firma una transacción o que usted cree que las transacciones no sirven para nada pues entonces cerramos todos el chiringuito en este parlamento y nos vamos a casa que cada uno tiene que ser coherente y ejercer su responsabilidad y estar a la altura obviamente de las circunstancias yo creo que aquí lo que le ha pasado al partido socialista es que ha cambiado de opinión y desde luego no se puede nadar y guardar la ropa como comúnmente se suele decir

usted hoy ha tenido que hacer un pequeño papelón porque ustedes tienen firmado un pacto

con el partido nacionalista vasco y ustedes ahí recogen lo que recogen pero la prueba más evidente que desmonta claramente y que no corrobora con los hechos
isiltasuna mesedez su posición en defensa de consignar las cantidades suficientes

a la enmienda del partido popular que pedía un aumento por importe de cuatro millónes de euros

de euros por lo tanto no me venga diciendo luego que a los ayuntamientos no les llega dinero cuando aquí hubo una enmienda concreta del partido popular para que realmente se incrementara la partida inicial de los presupuestos de veinte millónes quinientos mil euros

ustedes votaron que no igual que lo hizo el partido nacionalista vasco entonces no me diga que no hemos llegado a un acuerdo hemos intentado

el acuerdo que firmamos toda la oposición en esta cámara el pasado diez de octubre y ha sido imposible porque usted no se quería mover de su posición y no se quería mover de su posición porque usted sabrá lo que tienen entre manos qué quiere que le diga pero

que está defendiendo que los ayuntamientos tienen más dinero que pobrecitos los ayuntamientos que no les llega con el dinero que les llega del gobierno vasco

un acuerdo de octubre en el que expresamente se señalaba que el gobierno vasco si no llega con las cantidades que tiene inicialmente previstas aumente y amplíe inicialmente prevista que para ellos la partida de las ayudas de emergencia social es una ampliable y para eso también introducimos un artículo concreto

en la ley en el dos mil ocho que habla de que el gobierno vasco consigne las cantidades

de emergencia social sí efectivamente los ayuntamientos han tenido que poner más dinero si lo sabe muy bien el alcalde de vitoria que está aquí

porque no le ha llegado con la cantidad del gobierno vasco

su argumentación porque cuando llega el momento de la verdad usted es incapaz de reproducir

el acuerdo que usted firmó en octubre y es incapaz de votar como votó en contra de una enmienda del partido popular que pedía expresamente un incremento en cuatro millónes de euros bueno al final la iniciativa creo que es muy concreta señor maneiro también decirle que también usted nos puede decir lo que quiera pero usted no ha enmendado la iniciativa por lo tanto entiendo que usted

cuando vio la iniciativa se le quedaba muy bien porque no ha planteado ninguna enmienda sobre la que podamos transar y debatir y buscar

un apunte a la señora arregi que me parece muy bien que ahora están ustedes también en posiciones de gobierno

que lo que ustedes votaron en contra en octubre del dos mil trece es lo que planteaba la señora mendoza en la

que se acreditan en el concepto de ayudas de emergencia social y cuyos destinatarios cumplen con los requisitos de la comprobatoria

también obviamente no es lo mismo estar en una posición que otra como quedó
claramente patente en el acuerdo de octubre en el que ustedes no votaron a favor eskerrik asko garrido andrea

berriro mahai buru andrea señora sarasua tiene usted razón estamos de acuerdo en muchas cosas

estamos completamente de acuerdo ya sabemos cada vez si lo he dicho en la primera intervención

cada vez más paro soy plenamente conocedora de la situación de la comarca de la comarca que a mi me corresponde la cav y sé lo que está pasando claro por eso lo que no entiendo es cómo usted no ha querido firmar un acuerdo transaccional

sinceramente creo que se ha perdido usted en la dialéctica para no comprometerse y lo grave

tres líneas es muy cortito lo que planteábamos de ese acuerdo de octubre para transar el parlamento vasco insta al gobierno vasco a que en el proyecto de presupuestos en este caso dos mil quince se consigne la partida económica necesaria para atender a todas las solicitudes de las aes que cumplan con los requisitos establecidos para tal fin

el presupuesto pero luego llega el debate de presupuestos dos enmiendas de dos grupos diferentes y votan ustedes en contra en octubre sí en diciembre no y hoy no sabemos el qué ni lo uno ni lo otro se ha enmarañado

ni siquiera se ha esforzado en llegar a un acuerdo de transacción

señor maneiro exactamente igual se quejan de que aquí llegamos a acuerdos pero luego no se cumplen usted también se abstuvo en la enmienda a los prosupuestos

sí claro claro entonces qué nos quieren vender qué es lo que nos quieren vender aquí hay dos opciones

tenemos la herramienta que podemos utilizar enmienda presupuestos ya volveremos otra vez a meter este año

de que llegue el dinero para todos si no hay más

por qué se han perdido donde se han perdido si no hay más me ha parecido entenderle que ha dicho usted que el gobierno vasco valore después de un informe si hace falta más dinero

cómo que ahora el gobierno vasco si estamos diciendo nosotros que no llega nosotros aquí seguramente en nada vendrán con planes comarcales para la lucha contra la pobreza planes para luchar contra la pobreza infantil oiga pobreza infantil esos niños y esas niñas viven dentro de una unidad convivencial

muchos también van a solicitar a aes son esas familias que estamos hablando que no les llega el dinero no hagamos planes ni parches si tenemos ocasión hoy hemos perdido una ocasión de oro porque sí señora arregi no era el tema

nos parecía corto que se adelante el orden a enero porque si la orden no está como creemos que tiene que estar

y es lo que estamos haciendo y somos coherentes en octubre

a ser otra vez en los presupuestos siguientes es una discusión que hemos tenido más de una vez claro que no es un derecho subjetivo si ya lo sabemos pero si el año pasado amplió el gobierno la partida pues lo puede volver a hacer el año que viene

no en diciembre en junio para que tengan más tiempo los servicios sociales a ser posible para tramitarlo en fin es una pena es una pena porque

proposición de buenismo y hemos perdido una oportunidad importante y hemos dado un paso atrás

tremendo y la gente que está en la calle lo que vienen aquí a comparecer y nos piden soluciones nos están pidiendo soluciones y hoy aquí

le he dicho que en el fondo estamos de acuerdo las dos estamos de acuerdo los dos grupos estamos de acuerdo y usted sabe que es así y desde luego

porque cuando se viene a este estrado con conocimiento de causa pues se analizan las cosas que están pasando y ya he explicado lo que

y lo que no mejora empeora y sino lo iremos viendo porque los criterios

cuestiones hiperimportantes como tener en cuenta la cantidad que han aportado los ayuntamientos y el número de perceptores total de cada municipio eso lo obvia y también obvia a un cierto grupo de personas que igual no son perceptores de la renta de garantía de ingresos

hay que analizar las cuestiones que la publicación de la orden en enero está bien pero nosotros decíamos en diciembre ya lo hizo el gobierno socialista en el dos mil once la publicó en diciembre venimos aquí proponiendo lo que hemos hecho me dicen que soy incoherente pues no soy incoherente el grupo socialista no tiene porqué tener incoherencia tiene que tener propuestas y señora garrido dice usted que estoy desfondada y que he pegado un viraje pues eso es incompatible como es incompatible que usted esté hablando de lo que yo he dicho cuando usted no ha estado en esta cámara o ha estado hablando con el de al lado que a veces hay que escuchar también

pero sus críticas constructivas no destructivas porque usted es del partido popular y yo soy socialista a mucha honra me entiende y ya está bien

pero cuando me escuche y usted hoy no me ha escuchado lo siento pero creo que hay cosas

su iniciativa la proposición original

no vamos a arreglar el problema con la publicación de la orden porque detrás hay otras cuestiones que se llaman personas y que necesitan que haya una partida con una dotación suficiente

porque yo sé que el gobierno tiene voluntad pero dice que no tiene dinero sin embargo en fin hay otras cuestiones que son más prioritarias para ellos que las aes

que no dependamos el grupo socialista entiende que ha llegado el momento de la situación de crisis actual que no tengamos que depender de la voluntad de ningún gobierno que todo esté por escrito para el que vaya a pedir su aes pues en este momento coyuntural

sino mucha gente se va a quedar fuera que nuestra propuesta no les gusta a ustedes pues ya lo siento

bueno el pnv yo entiendo su posición pero ustedes o sea los socialistas tenemos que entrar

no todo tiene que ser textual entonces yo ya he dicho que si había posibilidad de barajar una modificación de manera que coyunturalmente

ese dinero pues nosotros entrábamos en el acuerdo pero ustedes tampoco se han mostrado muy partidarias

que con todas las horas que llevamos metidos en este parlamento y más esta semana yo no tengo más energías entiéndame y de verdad se lo digo o sea es que no podemos estar

que el grupo socialista quiere consensuar claro que sí y más en estos temas pero tenemos que debatir y analizar

lo dice el señor consejero al que yo respeto mucho dice

que las rentas de garantía el complemento prestación de vivienda no estaban creciendo

que las reflexiones deben ser tranquilas y que si se detectara la necesidad ya se vería lo cierto señor consejero

pero desde febrero de dos mil trece hasta hoy que han pasado dieciséis meses

numerosas resoluciones de extinción suspensión y denegación pues en mayo hemos batido un nuevo récord sesenta y cinco mil doscientos personas un diez por ciento más que hace un año por lo tanto

y bueno pues entonces lo que estamos evidenciando es que hay que hacer políticas públicas en materia de empleo y de sistemas de protección social

y que hay que darles prioridad en materia de empleo y protección social y por ahí

es posible que este gobierno no las cumpliera o sea que igual es posible que igual no le interese presentar nuevas iniciativas digo esto porque ha dicho antes que no firmaba una transaccional con el partido popular porque no merecía la pena ya que el gobierno pues no acostumbra a cumplir iniciativas

usted ha dicho pero en fin ustedes verán si firman una transaccional o no nosotros poco podemos decir porque es cierto que nosotros no hemos presentado una enmienda de totalidad

para intentar llegara algún tipo de acuerdo al menos con el partido popular que parece que por su discurso pues resulta que es el grupo político más sensible a esta cuestión bueno podríamos haber firmado quizás enmienda de transacción pero no ha sido posible porque upyd ha cometido el error de no presentar su enmienda quiero decir que nosotros votamos a favor de la transaccional de octubre del año dos mil trece y que presentamos enmienda al proyecto de presupuestos para incrementar la partida de las aes si no me equivoco al menos

que no votamos a favor de su enmienda pero sí votamos a favor de la enmienda del grupo popular en fin

durante los últimos meses y los últimos años creo que el grupo socialista efectivamente ha quedado de manifiesto que ha cambiado de opinión ha cambiado de posición

todas las ayudas de emergencia social me imagino que es porque hay un pacto político entre el partido nacionalista vasco y el partido socialista de euskadi que es un pacto político perfectamente respetable

el grupo socialista que tienen un acuerdo y que por lo tanto en esta cuestión no quieren incomodar al gobierno porque todos recordamos que hace algunos meses en octubre de dos mil trece la transaccional que se firmó y se votó la transaccional que se firmó es cuestión de prioridades y es cuestión voluntad política dejen de derrochar dinero público en cuestiones que no son prioritarias y atiendan las necesidades reales de los ciudadanos

de un campo de fútbol sin ir más lejos podíamos poner muchísimos más ejemplos pero esto ha sido debatido hace apenas dos semanas en este parlamento y esa iniciativa

diez millónes de euros tres coma tres millónes de euros anuales pues que no es importante que no es prioritario

hay mucho gasto superfluo a reducir y muchas prioridades que corregir yo no sé si sería posible en última instancia tratar de que ustedes llegaran a un acuerdo

iniciativa original y que también recoja aquello que se firmó en el octubre del año dos mil trece si fuera posible

a favor de ella el discurso de la señora garrido en su segunda intervención

muy correcto me ha convencido creo que usted ha tenido la capacidad de señalar perfectamente las incoherencias del resto de grupos y yo me he sentido perfectamente reflejado en esa intervención yo no sé si ustedes eso mismo lo dirían en el caso de que el gobierno vasco dependieran de ustedes no lo creo

pero hoy han hecho ese discurso yo lo he escuchado atentamente

aunque al señor maneiro le ha convencido plenamente la señora garrido pues ha sido muy congruente en su discurso yo le voy señalar alguna incongruencia una

muy concreta y por eso no presentamos ninguna enmienda porque estábamos de acuerdo con lo que solicitaba y hoy ha aprovechado para vistas las enmiendas del resto de grupos pues hablar de las aes en general que no era el discurso

que esa es la razón también por la cual usted señor maneiro no presentó enmienda porque a un tema tan concreto estando de acuerdo

se ha ido por otros derroteros por tanto no toca hoy hablar ni de la señora mendoza ni de lo que dijo

de eso ya hablaremos y ya hemos hablado también en este parlamento y seguiremos hablando estoy segura en cuanto a que su postura

coherente siempre en el tema de las aes solo decirle que ha sido coherente pero cuando se aprobó la ley

en ese sentido por lo tanto no puede pretender que tengan la misma consideración

aunque sí hablaba el señor maneiro de voluntad política pues la voluntad política este gobierno la ha demostrado porque incrementó la orden en dos millónes de euros más cuando el anterior gobierno mantuvo todo el rato exactamente el gobierno socialista sin incrementar ni un solo euro

tan preocupados por las necesidades y por la crisis que iba in crescendo etcétera pero no se puso ni un solo euro más

con hechos eh bilduri

en que no hay que caer en autocomplacencias tenemos un reto muy importante entre todos que es el desarrollo de la cartera de servicios sociales y que como ayer bien recogían y sí que expresaban en la comisión

necesita del máximo consenso posible y para ello saben que pueden contar con todos nosotros eta printzipioz besterik ez